tren de alta velocidad tren de alta mortalidad tren de alta precariedad

tren que no va a ninguna parte tren sin sentido tren que ya se ha cobrado nueve muertes que conozcamos

la salud laboral hau da lan baldintzak

arratsalde on legebiltzarkideok pues sí nosotros también esperamos que

para una reflexión nosotros vamos a aprovechar la ocasión para hacer la nuestra porque pensamos que las obras del tren de alta velocidad desarrolladas durante la última década se han caracterizado por una gran precariedad laboral que ha llegado

y creemos que hoy en día esta afirmación es o debería ser incuestionable jornadas de trabajo que exceden en mucho lo permitido por la normativa laboral y por los convenios colectivos ritmos de trabajo brutales y presiones a los trabajadores motivadas por las necesidades de cumplimientos de plazos por parte de las empresas contratistas y subcontratistas

y se han violado de manera constante derechos laborales tales como el disfrute de vacaciones las jornadas y los periodos de descanso

existen prácticas constantes de fraude en la contratación e incumplimiento de obligaciones con la seguridad social

de contrato por no hablar de la obligación de realizar tareas no correspondientes a la categoría del trabajador o sin la formación oportuna lo cual ha costado en estas obras más de una vida todas estas vulneraciones de derechos laborales junto a unas condiciones de trabajo de por sí ya precarias han supuesto una alta siniestralidad laboral y un evidente alto grado de inseguridad y falta de salud laboral en estas obras durante esta última década

los cientos de accidentes laborales de manera especial los graves accidentes

la contundente falta de seguridad y salud en las obras del tav en estos últimos años estas obras como conocen ustedes cuestan a las arcas públicas

y generan para las empresas contratistas cuantiosos beneficios privados por esta razón a nuestro grupo nos parece especialmente inadmisible

de tan alto coste económico se estén caracterizando por llevarse a cabo en condiciones laborales precarias y con constantes violaciones de los más elementales derechos laborales

se ha demostrado perversa y con nefastas consecuencias para trabajadoras y trabajadores una contratación pública con criterios casi exclusivamente económicos destinados a minimizar el coste en las empresas contratistas a costa de exprimir a las y los

una práctica que no es exclusiva de las obras del tren de alta velocidad nosotros ya lo hemos dicho en algún otro debate pero que ha sido evidente

que mueve miles de millónes de euros con sobrecostes cuantiosos con la participación de multitud uniones temporales de empresas contratistas subcontratistas sucesiones de empresas una práctica que ha sido evidente en unas obras sujetas a intereses políticos a necesidades propagandísticas de gobiernos y de partidos políticos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

gran descoordinación en materia de prevención de riesgos laborales con las más terribles consecuencias en nuestra opinión todas estas

han quedado demostradas a través de cientos de denuncias sindicales ante la autoridad laboral y ante las instituciones públicas

esta cámara parlamentaria denuncias que han sido negadas durante mucho tiempo por algunos partidos políticos por las empresas de la construcción y por la administración pública lo cual ha acabado

en los tribunales cuyas sentencias son en nuestra opinión las pruebas más evidentes de la existencia de esa explotación y vulneración constante de los derechos laborales en las obras del tren

durante demasiado tiempo sabemos que se suele decir que estas cuestiones hay que denunciarlas en los tribunales nos parece grave

nos parece que antes de obligar a los trabajadores a ir a los tribunales hay que resolverlas políticamente sabemos de la dificultad y el miedo de las personas trabajadoras a denunciar

un miedo porque saben ustedes que los trabajadores conocen perfectamente las consecuencias que puede tener para su futuro laboral denunciar estas cosas especialmente en un sector controlado por algunas grandes empresas y por qué no decirlo por algunas familias

en un sector donde los trabajadores se ven obligados a continuos cambios de empresa según acaban unas obras

otras y por lo tanto trabajadores que saben el riesgo que corren si son señalados como molestos o como denunciantes ante una situación así nosotras y nosotros pensamos que las instituciones y en concreto el gobierno vasco

especial en este caso proponemos hacer sendos diagnósticos serios y rigurosos sobre las condiciones laborales

diagnósticos cuyo objetivo sea tomar las medidas necesarias para acabar con esa situación y garantizar que cualquier empleo relacionado con las obras del tav sea un empleo digno y en buenas condiciones y por supuesto un empleo con todas las garantías en materia de seguridad y salud en el trabajo

se lo debía exigir hoy al gobierno deberíamos exigirle la toma de medidas especiales eso es lo que proponemos unas medidas especiales

sencillas hacer diagnósticos concretos específicos en profundidad sobre las condiciones reales en las que se trabaja en estas obras por qué el rechazo a una propuesta tan sencilla hay miedo a hacer ese esfuerzo hay miedo a realizar un trabajo de diagnóstico sobre las condiciones de trabajo

a alguien le da miedo conocer el resultado de esos diagnósticos o sobre todo que se conozca en la opinión pública

creemos que el resultado de esos diagnósticos sería algo que debiera interesar al departamento de desarrollo económico al de empleo y políticas sociales

a los tres departamentos desde nuestro grupo además queremos hacer hincapié en la necesidad de que el gobierno analice con las centrales sindicales cómo conseguir minimizar la subcontrataciones y cadenas de contratación en este caso en las obras del tav porque pensamos que son una de las principales herramientas empresariales para burlar

laboral de derechos de las y los trabajadores es un tema en el que nosotros solemos insistir bastante porque estas subcontrataciones precarizan hasta extremos inaceptables las condiciones laborales y ponen en riesgo la seguridad y la vida de trabajadoras y trabajadores la descoordinación en materia de prevención

ha quedado en nuestra opinión manifiestamente demostrada una y otra vez el gobierno tendría que poner todo de su parte para que fueran las mínimas posibles

y no se pretende hacer nada al respecto al contrario se facilitan y se fomentan

la transacción a la que hemos llegado eh bildu y nuestra coalición elkarrekin podemos era una transacción

que podía ser respaldada por el conjunto de la cámara en ella creo que se han eliminado los dos elementos que mayores problemas

que sustentan al gobierno no hacemos referencia a una paralización de las obras del tren de alta velocidad mientras se hacen esos diagnósticos que proponemos

sobre la eliminación completa de las subcontratas por eso pensamos que no atender a esta petición es reforzar los argumentos de desconfianza que hemos escuchado

sindicales ante la impunidad con que se cometen los abusos contra los trabajadores de manera especial en las obras del tren de alta velocidad

gracias señora presidenta buenas tardes a todos pues señor hernández yo no voy a apoyar esa enmienda de transacción

vasco pero creo que no por eso soy cómplice

sobre siniestralidad laboral es cierto que hemos hablado en muchas ocasiones en esta cámara pero volveremos a hablar y a debatir de este tema todas las veces que sea necesario porque para nosotros es una cuestión fundamental lo he dicho en todas las ocasiones en las que este tema se ha traído a esta cámara que el trabajo no debe ir unido en ningún caso ni a siniestralidad ni a malas condiciones de trabajo por ello

poner en marcha todos los mecanismos necesarios para evitar cualquier accidente cualquier enfermedad laboral o para garantizar unas buenas condiciones de trabajo

de la envergadura del tren de alta velocidad con varias

es imprescindible hacer inspecciones específicas eliminar las subcontratas creo que

algo que no es posible que se da en todas las obras en todas las instituciones que encargan obras

por el partido que estén dirigidas y desde luego que es necesario llevar a cabo esas denuncias cuando en esas subcontratas ello suponga una merma de la calidad en el empleo nosotros consideramos que en una obra de la envergadura de la obra del tren de alta velocidad es necesario priorizar y así lo decíamos en nuestra enmienda dentro de la actividad inspectora como me consta que se hace

precisamente por lo que decía porque existen muchas empresas por ser obras en las que son múltiples los agentes implicados y por lo tanto la prevención y la labor de la inspección llevando a cabo

es imprescindible como es necesario vigilar las condiciones laborales la contratación las jornadas que se ejecutan que se cumplen todas las medidas de prevención es necesario asegurar que no hay precarización yo en eso estoy de acuerdo con usted y es necesario hacer las denuncias que sean pertinentes y evidentemente

no tenga ninguna consecuencia por hacerla por lo tanto es necesario como decía que actúe la inspección creo que en eso estamos de acuerdo pero yo creo que aquí se han hecho una serie de afirmaciones y yo que a veces señor hernández le acuso a usted de ser maximalista y de ser

le ha pasado varios como décimos en natación varios largos

porque ha dado la sensación de que osalan y que la inspección laboral está absolutamente cruzada de brazos señora ubera bueno ustedes lo han dicho eh bildu durante mucho tiempo ha dicho

que osalan y la inspección de trabajo miraba

además de ser absolutamente injusto es radicalmente falso es que no es así no es así

la autoridad laboral la inspección de trabajo la autoridad en el ámbito de minas las diputaciones las empresas públicas donde también participan los sindicatos

visitas conjuntas a las obras y por lo tanto también a estas obras del tav

nosotros desde aquí queremos decir que todas esas muertes deben ser investigadas y nosotros estamos de acuerdo con esa afirmación de que no puede producirse una muerte más pero hasta donde yo sé

de las investigaciones realizadas la muerte de los dos últimos

y la del último trabajador fue un coche que no había puesto el freno de mano y aplastó al trabajador son muertes lamentables absolutamente lamentables y estoy de acuerdo con usted pero son muertes que no se debieron de manera directa a una falta de medidas de seguridad en la obra del tav lo cual no quiere decir que no haya que exigirlas todas

es verdad que al margen de estas dos muertes ha habido más muertes en las obras del tav muertes que condenamos

y que ojalá no vuelva a pasar ninguna más pero que cualquier muerte o cualquier accidente laboral solicitamos

para que esto no vuelva a suceder y no solamente una muerte sino que no haya que lamentar ni un accidente más por eso como usted pedimos que se vigilen las condiciones en las que se realizan los trabajos analizando las condiciones de contratación los horarios

la maquinaria y los medios de trabajo que se utilizan tras este análisis si fueran precisas que se pongan en marcha de manera inmediata

las medidas que permitan que los trabajadores del tren de alta velocidad hacen su trabajo en condiciones de seguridad y que se cumple toda

laboral y en todos sus aspectos ese era el contenido de la enmienda que nosotros hemos presentado y que finalmente ha sido incorporado como digo a esa enmienda que hemos firmado con el partido nacionalista

la iniciativa propone eso propone una inspección propone y eso se lleva también a la enmienda un análisis y diagnóstico porque eso es la inspección un análisis y diagnóstico

que puedan afectar a la seguridad y al trabajo prestado por los trabajadores del tren de alta velocidad yo no tengo ningún miedo a ese diagnóstico ningún miedo la cuestión es quién debe realizar

ese estudio sobre las condiciones de contratación los horarios las medidas de seguridad la maquinaria todas esas cuestiones

objeto de la labor que tiene que llevar acabo la inspección no hay que inventarse nada

la labor de la inspección y estamos de acuerdo en que esa labor

en caso de que sea necesario que se priorice o que se siga priorizando porque ya se está realizando

pero no es necesario que el gobierno vasco usurpe una función que es la propia de la inspección de trabajo porque la cuestión discrepante es quién en la iniciativa se propone que esa inspección se haga por parte del gobierno vasco y nosotros con ese aspecto es con lo que no estamos de acuerdo y es lo que queríamos reflejar en nuestra enmienda

que la inspección de trabajo y osalan para la prevención de riesgos laborales y ustedes han eliminado es cierto de la enmienda uno de los aspectos que yo creo que radicaba en el fondo y de hecho la señora ubera lo ha dicho

de las obras del tav ustedes decía la señora ubera que no son viables social y económicamente no sé socialmente no sé

hay otra mucha parte de los vascos que consideran que el tren de alta velocidad es muy viable y que quieren esa obra y que quieren que el tren de alta velocidad llega a euskadi usted lo ha calificado como una obra sin sentido para otros vascos

mucho sentido y yo creo que una de las iniciativas que ustedes uno de los objetivos de esta iniciativa y ustedes no solamente lo hacen con esta también hay otras iniciativas

las obras del estadio san mamés no pidieron la paralización de las obras de san mamés

no ahí se pidió que se vigilase pero en ningún momento pidieron la paralización de esas obras mientras se analizaba no ustedes piden la paralización de las obras del tav igual porque las consideran faraónicas como las califica

se habían impuesto unas obras faraónicas que solo interesaban a las elites económicas y políticas para seguir manteniendo y aumentando sus beneficios mientras genera pobreza en las personas trabajadoras y unas infraestructuras que destruyen el medio ambiente y desequilibran el territorio y por ello lab exigía la paralización de las obras que es lo que ustedes exigían esto en su iniciativa original pero no es ahora ya en dos mil catorce

y ustedes siempre siempre se han opuesto a la construcción aduciendo el gran impacto medio ambiental

en la diana de aquellos a quienes ustedes siguen sin condenar en la diana de eta

con los que se ha tenido que ejecutar la obra la banda terrorista puso a las

durante mucho tiempo porque nosotros aquí no tenemos al revés nos sumamos a esa condena y a esa petición de investigación de todas los trabajadores que han muerto en las obras del tav ustedes condenan el asesinato de uria su empresa altuna y uria trabajaba en uno de los tramos y fue asesinado por ello y aquel

no quisieran participar en la obra o recelasen de participar en esa obra y muchas

tanto de sus empresas como de sus trabajadores para evitar atentados y eso también supuso un sobrecoste

hablaba usted señora ubera pues los atentados de eta y las amenazas de eta también supusieron un sobrecoste y de eso también hay que hablar cuando uno

de eso también señora ubera y por supuesto que hay que debatir de lo que nos ha traído aquí que son los accidentes laborales que se produzcan en las obras de las condiciones laborales

subcontratación sí pero con garantías las condiciones de trabajo que sean unas condiciones legales no sean unas condiciones precarias hay que actuar entre todos y hay que tomar
medidas entre todos como usted señala en la iniciativa señora ubera para que no amaitzen joan sí acabo ya señora presidenta para que no se vuelva a producir

trabajador para que eso no suceda nunca más eso es lo que pretendíamos con la enmienda que hemos puesto a la iniciativa que eso se haga pero que lo haga quien es competente para ello nada más muchas gracias

hoy vamos a hablar de siniestralidad laboral y de medidas de prevención de riesgos laborales en las obras del tav señala el grupo proponente de la iniciativa que recientemente

y como consecuencia del mismo pide que se realice un informe un estudio diagnóstico en profundidad de las condiciones de seguridad de los trabajadores del tav

se definan las conclusiones que se saquen dentro del mismo y se presenten una vez finalizado en

de la consejera de trabajo y justicia y mientras tanto mientras se realiza ese estudio diagnóstico lo que piden es que se suspendan las obras del tav

tengo que manifestar que no estamos de acuerdo con la iniciativa presentada por las razones que voy a exponer a continuación la prevención de riesgos laborales desde luego es un derecho humano no tiene la consideración de derecho fundamental pero forma parte de los principios rectores de la política

mi grupo parlamentario los socialistas vascos creemos que hay que adoptar todas las medidas necesarias con el fin de evitar en la medida de lo posible los accidentes laborales cualquier accidente laboral sea calificado como mortal o como leve pero hay que adoptar las medidas adecuadas para conseguir

en primer lugar hay que investigar cuáles son las causas de dichos accidentes y adoptar las actuaciones de control que se deban de llevar a cabo con el fin de evitar que se puedan volver a producir en el futuro mirando las causas de estos dos accidentes señalar que el primero

antes con la cabeza según datos de la inspección de trabajo el primero fue derivado de un infarto

y el segundo accidente se produjo cuando el trabajador cuando aparco el vehículo

olvidó colocar el freno de mano y aunque no había prácticamente rampa

y atropelló al trabajador accidentado desde luego sentimos ambos fallecimientos pero es que ninguno de estos dos

se puede decir que se ha producido por falta de medidas de seguridad en la del tav son muy desgraciados y desde luego lo sentimos pero no podemos decir que como consecuencia a esas faltas de medidas de seguridad hay que paralizar

que solicitan ustedes sin embargo ustedes a pesar de saber que eso es así lo que piden es la paralización inmediata de las obras del tav hasta que se finalicen esos informes pues yo les digo que ambos accidentes mortales se hubieran producido exactamente igual con la realización de este informe diagnóstico o no porque un infarto no puede prever la empresa

evidentemente es considerado como accidente de trabajo y el segundo

porque se le olvidó al trabajador accidentado el echar el freno de mano y tuvo esas consecuencias desgraciadas

le da lo mismo cuáles son las causas de los fallecimientos o si ha habido falta de medidas de seguridad o no

quieren hacer ver una situación que no es real que no es como ustedes la han planteado y ustedes lo único que persiguen es lo que han perseguido siempre

aprovechando esa situación lo que piden es paralicemos las obras del tav que es lo que llevan pidiendo hace muchísimos y no sé yo pienso por esa filosofía por qué piden solo la paralización de las obras del tav accidentes mortales ocurren en todas las empresas van a pedir a pedir la paralización de cualquier trabajo en cualquier empresa por esa filosofía porque según su planteamiento sería la única forma

ningún accidente mortal nunca más sin embargo he de ponerles de manifiesto para su tranquilidad

todos los accidentes mortales graves y muy graves que se producen en la comunidad autónoma vasca

y con todas sus consecuencias y se lleva a cabo desde la inspección de trabajo

de las contrataciones laborales y jornada en las obras estos análisis permiten tomar de prevención con el fin de evitar que vuelvan a suceder y también sirven para elaborar guías de prevención de riesgos laborales que se llevan a cabo entre técnicos del propio osalan y de empresas importantes del sector

autonómico como nacional como pueden ser guías de redes de seguridad de cofrados guía de seguridad en la ejecución de túneles de seguridad en zanjas guías de seguridad en la construcción de puentes en la actualidad se está elaborando una guía

que estará ultimada para finales del dos mil diecinueve y una vez finalizado esta se llevará a cabo

de reparación de vías es que somos pioneros desde hace muchos años a nivel en este trabajo en especial en el sector de la construcción tan importante para servir de guía en la prevención de riesgos laborales y vamos a seguir llevando a cabo

están publicadas y son de acceso general a través de la web de osalan la conclusiones y medidas a adoptar para eliminar los riesgos

luego para poder realizar las evaluaciones de riesgos son estas evaluaciones de riesgos y las planificaciones preventivas las que son responsabilidad de las propias empresas que deben tener presentes y aplicarlas y además tenerlas actualizadas y dentro de las obras de construcción también existen los coordinadores

nombrados porque así lo obliga también la ley la inspección de trabajo se encarga de controlar estas evaluaciones de riesgos y planificaciones preventivas y si alguna irregularidad

pertinentes y por otro lado aparte la inspección de trabajo planifica campañas de actuación inspectoras

vinculadas a la comisión de seguimiento de prevención de riesgos laborales en grandes obras de infraestructura

las administraciones públicas en el país vasco y durante el año dos mil dieciocho se han realizado cincuenta y seis visitas conjuntas de inspección de trabajo

aparte de visitas individualizadas que han podido de efectuar desde osalan desde la inspección de trabajo y la dirección de minas veintiuno en bizkaia y treinta y uno en gipuzkoa porque no existen

en álava como consecuencia de estas actuaciones en los casos de incumplimiento

hacer requerimientos para que sean subsanados y actas de infracción y se tienen controlados cuales han sido los principales incumplimientos detectados en todas estas actuaciones

que le he hecho referencia que se reúne con periodicidad

se toman medidas y se toman decisiones que se siguen teniendo en cuenta en las siguientes visitas programadas y la única forma

para la seguridad de los trabajadores y este riesgo grave e inminente según el artículo veintiuno de la ley de prevención de riesgos laborales esa paralización

la puede llevar a cabo bien el empresario los representantes legales de los trabajadores los propios trabajadores afectados y la inspección de trabajo desde luego

mientras no se cumplan las medidas que se han exigido dentro de la misma pero desde luego el parlamento vasco no tiene ninguna facultad para

de ningún tipo de obras los procedimientos adecuados son otros es llevar a cabo ese trabajo continuado de inspecciones que se hacen con valentía y se hacen continuadamente yo no estoy de acuerdo en lo que usted ha planteado señora ubera de que no se va de que no se efectúan actuaciones de que no se hacen con valentía porque sí se realizan se realizan de una forma continuada sistemática y responsabilidad y de la misma se derivan una serie de actuaciones que se le exigen a las empresas y se evitan también muchas cosas con todas esas medidas que se hayan podido plantear porque nunca se puede medir lo que se ha podido evitar porque como ya no se ha producido

no se puede recoger

pero son porque las actuaciones se realizan y muchas y son buenas por eso no estábamos de acuerdo con lo que ustedes piden no es necesaria la realización de ese estudio o ese informe diagnóstico

esas evaluaciones de riesgos y esas planificaciones preventivas

de qué sirve hacer un estudio diagnóstico ahora mismo si dentro de un mes las circunstancias son diferentes entonces estamos haciendo estudios diagnósticos todo el día y no hacemos obras de construcción porque nos dedicamos a hacer estudios diagnósticos continuamente

pues no eso no es así para eso están las evaluaciones de riesgo y las planificaciones preventivas y eso lo que tiene que tenerlo

efectivamente se esté cumpliendo y adoptar las medidas necesarias por eso evidentemente

a votar a favor de la enmienda transaccional porque sigue por la línea que nosotros consideramos que se tiene que ir que es seguir analizando y realizando esas
investigaciones de los accidentes de trabajo que se producen siempre ya le digo amaitzen

graves y muy graves y gran parte de los leves para que se continúen planificando

que van a la comisión de seguimiento de prevención de riesgos laborales y para que se continúen priorizando también esas inspecciones dentro de las obras del tav mirando no solamente las medidas de seguridad y salud laboral

porque no se produzca un fraude laboral y se cumplan también las jornadas
laborales que se tienen que cumplir eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak

sin duda es importante que se pongan todos los medios que sean necesarios para que las condiciones laborales sean adecuadas para garantizar la salud y seguridad en el trabajo eta

guztion zeregina da así todos y cada uno de los agentes implicados deben de ejercer de manera responsable los cometidos que le corresponden empresas sindicatos las y los trabajadores y por supuesto la administración como digo en la medida en que le corresponde

es esencial el impulso la implicación institucional sin duda y en ese camino ha estado y está

con un firme compromiso con el desarrollo de actuaciones que den respuesta a las necesidades y los problemas de la sociedad compromiso firme y trabajo constante con el objetivo de garantizar que se den los niveles de seguridad y salud que sean precisos utilizando para ello las herramientas que están a su alcance como la inspección de trabajo

aldera fruto de este compromiso el gobierno vasco con la promoción de la salud y seguridad está el reforzamiento que se está realizando a la inspección de trabajo de la que hemos hablado ya en reiteradas ocasiones en esta cámara un esfuerzo y un refuerzo sin duda importante

más y más precisas actuaciones dirigidas a controlar el cumplimiento de la normativa en esta materia

laboral sobre todo si es con resultado de fallecimiento los esfuerzos que se hacen siempre nos van a parecer insuficientes y escasos por eso hay que seguir avanzando en dotar a la inspección

para realizar su labor de la mejor manera posible en aras a asegurar el cumplimiento de la normativa laboral de forma efectiva y de evitar condiciones poco dignas y de inseguridad para las y los trabajadores de todas las obras como las del tav para todos las y los trabajadores sean de aquí y sean de donde sean por supuesto hay que seguir trabajando para

del servicio de inspección servicio que realiza sus funciones inspectoras en base a la planificación anual que tiene en la cual se recogen específicamente también la programación detallada de las visitas de control e inspección a las obras del tav en sus diferentes tramos

la comisión de seguimiento de grandes obras públicas a la que ya se ha hecho también referencia aquí en la cual se especifica

a realizar en las obras públicas como el tav de forma conjunta por parte de las y los inspectores técnicos de osalan y en su caso cuando procede también participan personal técnico de la dirección de minas del gobierno vasco

las inspecciones que se realizan son exhaustivas la inspección cumple su función porque es a la inspección a la que le compete y le corresponde

y si como consecuencia de las inspecciones que se realizan se detectan incumplimientos que se detectan

o deficiencias encontradas y en siguientes visitas se procede a comprobar su cumplimiento y se tendrá que ser riguroso evidentemente y totalmente de acuerdo y compartimos con ello hay que ser muy riguroso en la exigencia del cumplimiento de toda deficiencia detectada y de hecho si en cualquier inspección se detecta

el inspector determinará si así lo considera la paralización del concreto

hay que actuar con rigor y con contundencia sin ninguna duda velando absolutamente por la seguridad

pero también con sentido de la proporcionalidad es sin duda preocupante que se produzcan accidentes laborales sin duda como lo es que se produzcan accidentes de tráfico y en estos casos las medidas que se plantean cuando se produce un accidente no es cerrar una autopista lo que se hace es

se llevarán a cabo las medidas que se consideren en ese momento más oportunas incidir en mejorar la señalización se incidirá en la seguridad en mejorar las infraestructuras en la medida en que sean mejorables

habrá que tomar las medidas que sean necesarias para garantizar que situaciones desde luego no deseadas por nadie se vuelvan a producir

a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales y de las medidas en materia de prevención de riesgos laborales también en las obras del tav

sino también a través de osalan otra de las herramientas fundamentales con las que cuenta el gobierno para seguir avanzando con este objetivo y también se ha dicho aquí

que se producen para conocer qué ha pasado y por qué ha ocurrido

a ocurrir para evitar que vuelvan a ocurrir sin obviar y

se produce como consecuencia de la falta de medidas de seguridad en ocasiones

o descuidos en todo caso todo fallecimiento es lamentable

poder proponer determinar medidas preventivas que en la medida de lo posible

la gestión de las empresas que se han visto implicadas en esta materia

en definitiva bueno yo ya voy a ir terminando insistiendo

desde nuestro punto de vista no es necesario hacer un análisis y un diagnóstico específico porque es una cuestión que está en continuo análisis está en permanente revisión

hay que continuar y en estos términos hemos planteado la enmienda

el grupo popular este es el camino que entendemos que debe de seguir optimizando la utilización de estas herramientas incrementando las actuaciones de la inspección de trabajo

laboral tanto en materia de condiciones laborales como en materia de prevención de riesgos laborales e investigando y analizando todos los accidentes que se producen a fin de poder sacar conclusiones que permitan seguir avanzando en mejorar esta realidad y

expresando nuestra solidaridad con todas las personas que han tenido la mala fortuna de sufrir un accidente laboral y desde luego con todas aquellas bueno que han fallecido y sus familias besterik gabe eskerrik asko

sabes lo que han acordado primer punto que sigan segundo punto que continúe tercer punto a que continúe si continúan haciendo lo mismo

qué va a cambiar qué piensan que puede cambiar

en el país de las maravillas y si siendo pioneros señora sánchez pasa todo esto no quiero ni pensar

sabéis de qué estamos hablando parece que no que no se dan cuenta que no son conscientes bost minututik

por favor por favor qué estamos haciendo o el gobierno qué está haciendo pioneros eta gero

hacer un diagnóstico y ojo un diagnóstico para que se tomen medidas en base a ese diagnóstico sobre la realidad de trabajo en las obras del tren de alta velocidad bueno pues me voy convencido

que hoy he escuchado aquí porque un infarto al corazón en una obra se ha descrito prácticamente igual que lo suele describir la patronal

como que eso no tiene nada que ver con las condiciones de trabajo precisamente porque muchos accidentes de trabajo no tienen que ver directamente como se ha dicho con algunas faltas o con las faltas de prevención de riesgos laborales

con las propias condiciones de trabajo y por eso hay que analizar las condiciones de trabajo porque no basta con conocer que se cumple lo que la normativa dice que en una empresa en un centro de trabajo o en una obra tiene que estar

la carretilla y por las que deben ir los trabajadores peatones

y producirse situaciones de riesgo por las condiciones de trabajo y esto tiene mucho que ver

por eso me parece que me voy más convencido de que hay que hacer

una buena propuesta este domingo yo tenía comida con la cuadrilla después de la behobia

por alguna de las razones que ha explicado la señora ubera anteriormente y antes trabajó lógicamente muchos años a este lado del bidasoa

decía que cuando él tiene que estar con la grúa

y que sabe que son un riesgo para las condiciones de trabajo pero no es responsable porque él sabe quién tiene detrás apretándole si no hace esas cosas y él sabe dónde puede acabar si no hace esas cosas y él sabe que si luego tiene que ir a buscar trabajo

se hablan entre ellas se conocen saben los riesgos que hay para denunciar estas cosas por eso es importante no solo decir que hay que cumplir la prevención de riesgos laborales muy bien eso es muy importante está muy bien

de hacer un diagnóstico de las condiciones reales en una sobras que se ha constatado en el tiempo

una década que ha habido vulneraciones graves de los derechos de las y los trabajadores de todo tipo

que se ha hablado de cobrar yo antes he hablado de cobrar salarios por debajo

que corresponde y todas estas cuestiones tienen que ver con la seguridad y la salud en el trabajo que desde luego para mí son una misma cosa

que las condiciones de trabajo y nosotros no vamos aceptar que los impactos de miocardio no tengan que ver con la seguridad y la salud en el trabajo ni incluso el que a un trabajador se le olvide poner el freno de mano desconozco ese caso concreto el estudio que ha hecho osalan del freno de mano

que el freno de mano se olvida poner a un trabajador que lleva trece horas trabajando y eso tiene que ver con las condiciones de trabajo y para eso sirven este tipo

lo hemos vivido mucha gente yo ya lo he dicho alguna vez yo he cometido con la carretilla temeridades que no se deberían de cometer

por lo tanto este tipo de medidas que además creo que no tienen un coste económico importante para el gobierno son medidas que perfectamente

y la subcontrataciones y con esto termino señora llanos usted dice subcontrataciones sí pero en condiciones dignas yo

en las cadenas de subcontrataciones porque están ideadas precisamente para tener condiciones precarias y para ahorrar costes a las empresas y a los grupos de empresas

es denunciado por todos los sindicatos imposible por lo tanto pues yo me voy convencido de que más convencido de lo que vine de que

señora presidenta señor hernández otras veces le suelo decir que es usted

usted no ha dicho que no haya que no se vigile ha dicho que se tiene que vigilar más

usted ha dicho que hay que hacer un diagnóstico y

entendido en el sentido de vigilar no solo no solo el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que también

de trabajo de las condiciones de horarios de las condiciones incluso económicas o sea todo eso forma parte

de lo que tiene que vigilar en esta obra concretamente porque es la que es objeto de la iniciativa y en todas las demás

los dos casos o sea yo le digo que puede parecer a primera vista que nada tienen que ver con el cumplimiento de medidas de prevención

con las condiciones laborales en las que se estaba desempeñando ese trabajo y yo estoy de acuerdo con usted pero en lo que puedo discrepar o en lo que podemos discrepar es en cómo llevar acabo esa inspección usted dice que tiene que hacerse un diagnóstico por parte del gobierno vasco un diagnóstico específico

yo lo que le digo es que el objeto de ese diagnóstico o de esa vigilancia que usted señala que se tiene que realizar yo estoy de acuerdo con él pero yo creo que

lo que tienen que hacer las autoridades que ya son competentes y que tienen que realizar eso y si no lo realizan

pues habrá que denunciar que no se realiza y habrá que poner todos los medios adecuados para que se realicen y usted decía que esas cuestiones

o en las que osalan mire para otro lado pero si así fuera a esas empresas y usted lo sabe mejor que yo porque es sindical está

y usted sabe como yo que igual que existe

en el derecho penal en el derecho laboral es in dubio pro laborem es decir en caso de duda a quien se da la razón es al trabajador y no me parece mal y no me parece mal pero es así quiero decir que oportuno como usted dice que no haya que recurrir a denunciar ante los tribunales este tipo de cuestiones

y que sea pertinente que la inspección de trabajo haga en obras como estas inspecciones específicas que se están realizando

no no no siempre hay un ámbito de mejora y evidentemente si se produce una muerte o se produce un accidente laboral claro que hay ámbito de mejora si se produce un incumplimiento de condiciones laborales

en sueldos en condiciones de trabajo hay ámbito de mejora evidentemente pero yo lo que digo es

que es objeto de crítica y de peticiones por tierra mar y aire de su paralización en este caso concreto del tav no hagamos no no es una obra de gran envergadura como tal hay que tratarla y hay que hacer inspecciones que se cumpla todas las condiciones como en todas las demás

como regla general que en la subcontratación no habrá que vigilar porque aquí ya ha habido iniciativas al respecto

y que no se aplique el contrato el convenio laboral del país de origen precisamente porque en muchas ocasiones eso producía que los trabajadores tuvieran condiciones laborales peores que los trabajadores españoles trabajando en el mismo centro de trabajo y en el mismo lugar de trabajo quiero decir que yo en eso estoy

y señora ubera porque grite más no tiene más razón

porque le recuerdo yo que soy aquí que parezco la defensora del metro

casi todo el trazado discurren por túneles qué hacemos

los mineros trabajan en túneles

hay bastante movimiento y contestación de los trabajadores

pero es que usted aquí de verdad ha sido vamos ya no no ha venido a decir que vivimos en la selva en lo que a condiciones de trabajo y en vigilancia y en inspección de trabajo de refiere

no sé si con los helicópteros o no pero vamos a ver yo creo ya le he dicho hay un ámbito de mejora por supuesto porque siempre que se produce un accidente o un incumplimiento laboral

hay que actuar pero de ahí a parecer que aquí se está de brazos cruzados y no se hace nada creo

y usted hoy aquí lo ha tratado como si fuese nada un caminito estrecho fácilmente sorteable por eso yo creo que en la iniciativa que hemos tratado ya se reconoce que hay que seguir trabajando y creo que hay que denunciar pero reconociendo que hay cosas que se hacen
y que están bien hechas nadas más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

vamos a ver evidentemente desde mi grupo parlamentario

ni más accidentes aunque sean calificados como muy graves o graves o leves evidentemente pero ustedes han dicho o consideran que la única panacea para evitar que eso se pueda producir es que se haga ese estudio diagnóstico y que parece que con ese estudio diagnóstico se va a resolver absolutamente todo

como ya le he dicho si se hace una investigación de cada accidente mortal muy grave y grave que se miran absolutamente todos por parte de osalan y de inspección de trabajo

es un estudio diagnóstico de lo que ha pasado en ese accidente y se mira

que cualquier tipo de circunstancia que se haya producido porque también los infartos se investigan por si acaso porque aunque se produzcan durante la jornada laboral

por si es derivado de alguna causa que ha podido ocasionar ese infarto también se investigan pero muchas veces evidentemente

no puedes llegar a la conclusión de que ese infarto ha podido ser derivado

de circunstancias que haya en el trabajo por si acaso también se investiga pero evidentemente

es decir que hay unas faltas de medidas de seguridad evidentes es catastrófica la situación porque en esos casos la realidad es

evidentemente cada informe de accidente muchas veces por eso lleva mucho tiempo porque se realizan unas investigaciones muy serias de cada accidente que se produce y tienes que ir a lo mejor varias veces al centro de trabajo y volver a reproducir como se ha producido el accidente para ir buscando

o sea que es un trabajo bastante completo y bastante

por parte de la inspección de trabajo y por parte de osalan en cada accidente mortal muy grave y grave que se produce en esta comunidad autónoma y también en los leves

y se recogen qué causas han podido ser y se recogen qué medidas se tenían que adoptar

y se pide recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad si es necesario para

del trabajador afectado o del trabajador fallecido entonces no podemos admitir que usted diga que no se hace absolutamente nada porque sí se hace mucho pero consideramos que ese estudio diagnóstico es que no es necesario no va a aportar nada nuevo porque ya se investiga cada uno de esos accidentes

para hacerlas conjuntas y se llevan a esa comisión los resultados a esa comisión de seguimiento y en esa comisión de seguimiento se evalúan se toman decisiones y se mejorar y cambiar y adoptar las medidas que consideren pertinentes y ahí están representados la administración

se hace un seguimiento muy particular a esta obra por la envergadura

y se ha mantenido durante muchos años evidentemente lleva diez años pues esta comisión se sigue manteniendo mientras

es bueno es importante y no admito que digan que no se está realizando absolutamente nada porque no es así

seguir realizando porque ya he dicho que la investigación de todos esos accidentes se realiza y por supuesto también dice que se continúe planificando porque es que se planifica es que no vamos a poner que se planifica a partir de ahora porque se viene planificando

conjuntas y también que se continúe priorizando el estudio no solamente de las medidas de seguridad sino también las condiciones de trabajo horarios laborales etcétera etcétera porque también es importante aparte de medir de comprobar qué

etcétera también es importante ver que no existe una precariedad laboral corregir

situaciones irregulares que se vean ya le comentamos

en indefinidos por las actuaciones de la inspección de trabajo la inspección de trabajo comprueba

y en una investigación de un accidente de trabajo se mira absolutamente todo y cuando no se han producido accidentes también porque en esas visitas periódicas se mira absolutamente todo se comprueban horarios se comprueban contrataciones se comprueban medidas de seguridad y salud laboral entonces

muchas cosas y creemos que tienen que seguir haciéndose qué se pueden hacer más pues también como decía la señora llanos pues podemos hacer más y en eso yo puedo estar de acuerdo pero se está haciendo y mucho
y entonces hay que poner en valor también lo que se está haciendo eskerrik asko sánchez anderea

señora ubera sabemos perfectamente de lo que estamos hablando y en ningún caso hemos minimizado la preocupación y la importancia que para nuestro grupo tiene

total y absoluto de las adecuadas condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales

yo creo que ha llegado a decir que el personal de la inspección y de osalan no actúa con la suficiente profesionalidad no sé seamos serios a mí me parecen afirmaciones

montones de cosas se está avanzando mucho hay mucho margen de mejora hay mucho que hacer pero lo que no se puede es

la valía profesional de un cuerpo de un grupo de personas que están continuamente

trabajando en que estas cosas no ocurran no sigan ocurriendo

de que vuelven a aprovechar la oportunidad cualquier oportunidad

su rechazo a unas obras con la que no están de acuerdo desde sus comienzos

se han puesto sobre la mesa en esta cámara multitud de iniciativas en relación con el pleno y ya hayan sido ustedes o cualquier otro grupo siempre aprovechan la oportunidad y la ocasión para pedir la paralización de una obra

y lo reconocemos está habiendo demasiados accidentes con que

y lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir el velar por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales el velar por unas adecuadas condiciones de trabajo y sobre todo por encima de la prevención de riesgos laborales es una responsabilidad compartida

los empresarios tienen mucha responsabilidad tienen la obligación de poner todos los medios que sean necesarios para garantizar

necesarias de que haya unas adecuadas condiciones de trabajo los trabajadores y trabajadoras también tienen su parte de implicación y responsabilidad los sindicatos como

la figura de las y los delegados de prevención que tienen un papel fundamental también

por el seguimiento del cumplimiento de la normativa laboral en todos sus ámbitos y si ustedes tienen tan claro como hoy nos han dicho aquí que se han producido incumplimientos

entiendo que también sabrán en relación a qué empresas son

pues denúncienlo pónganlo sobre la mesa y

señor hernández en un principio en su enmienda sí que hablaba de suprimir la subcontratación luego en la transacción que han acordado con euskal herria bildu bueno parece que

de reducir evidentemente la subcontratación es una figura que está contemplada y que muchas veces

de la envergadura de la del tav con la complejidad que tiene en la cual es necesario contar con personas especialistas en muy diferentes ámbitos y gremios con lo cual es inevitable y es lógico además que se recurra a la contratación en todo caso no sé si conoce usted alguna empresa que pueda tener en su estructura

llevar a cabo una obra de esta envergadura con adecuadas condiciones

la subcontratación por sí misma no es mala yo creo que a veces la demonizan también no

y habrá que hacer todos los esfuerzos por vigilar para que todas las empresas que participan

realmente con las condiciones adecuadas en materia de prevención de riesgos laborales

y habrá que insistir y reforzar los mecanismos para ello y en ese sentido estamos de acuerdo

se está haciendo a través de osalan y de lo que se trata es de reforzar estos mecanismos que ya tenemos para que realmente

suficiente para evitar que estas condiciones precarias

las mejores condiciones laborales para poder desarrollar su trabajo de la mejor manera posible eskerrik asko

las razones de esto son muchas y variadas pero una de ellas la ha dado también la señora otamendi es la ley de la selva de la oferta

que la ciudadanía que cada persona cada familia cada ciudadano y ciudadana una vivienda digna pero también lo es fruto de la mentalidad que tenemos en el país también pero también lo es porque la vivienda protegida todavía representa un parque muy

los programas de intermediación de alquiler todavía no consiguen año tras año llegar a los objetivos que están marcados este año se ha puesto el gobierno a sí mismo unos objetivos

no sabemos tampoco muy bien cómo lo va a hacer en esta transacción

para ello y ojalá se cumpla y ahí estaremos también para señalarlo pero todavía estamos lejos

es una realidad que se contrapone con ochenta y cuatro mil personas en euskadi que necesitan una primera vivienda con sesenta y dos mil personas que están apuntadas en etxebide el ochenta por ciento de ellas

una vivienda en alquiler por tanto es urgente primero ampliar el parque segundo movilizar la vivienda vacía y tercero garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y creo que estamos de acuerdo que tampoco lo digo yo que también por ejemplo lo dijo el ararteko

problema al desarrollar la ley es la vivienda deshabitada lo tenemos aprobado en este parlamento

y en julio de este año dijimos al gobierno que fuera haciendo los

a un acuerdo que pone ya por fin un plazo concreto son nueve meses empieza mañana cuando entre en vigor el acuerdo nueve meses ni más ni menos tenemos que desarrollar esta herramienta que es importante para el desarrollo de la ley

el alquiler desde el gobierno vasco para satisfacer esa necesidad de vivienda pública que hay vuelvo a decir y vuelvo a pedir y nuestra mano la vuelvo a ofrecer al gobierno para que lidere este proceso

de la vivienda deshabitada ayudando con el registro de viviendas vacías con la regulación

forzoso pero lo tiene que liderar el gobierno no puede depender tampoco de la voluntad de uno o de otro ayuntamiento tiene que liderarlo el gobierno eta hau da

pero que pensamos que evidentemente lo mejor y en eso seguiremos trabajando aquí y donde haga falta sería limitar por ley

limitar por ley el mercado de alquiler pero mientras podamos hacer eso es una medida que puede ayudar a sensibilizar que puede ayudar a trabajar en la regulación del precio del alquiler y que además que es una herramienta que en ese trabajo que tiene que presentar antes de fin de año ante el órgano de coordinación tributaria del

del alquiler creemos que es una medida que puede servir ese índice de precios de alquiler que lo que

de la media de precios en base a los precios de mercado en base también

de fianzas del gobierno vasco en base a las características del edificio y de la vivienda que ese tipo de índices sirva también para

pública por tanto después de este debate que

en el camino creo que hemos sido capaces y yo creo que eso está bien y hay que decirlo de llegar a este

muy concreto de seis puntos y que tiene plazos plazos sobre los que vamos a estar encima ese informe que tiene que hacer el gobierno vasco

ayuntamientos ese informe del primer trimestre de la planificación del desarrollo de la ley de vivienda que ya lo teníamos acordado en el año dos mil diecisiete en octubre pero bueno ahora primer trimestre de dos mil diecinueve último día de marzo estaremos esperando o no si llega antes pero si no estaremos esperando el último día para que se entregue

también para el derecho subjetivo a la vivienda ahí estaremos atentos sobre todo a dos cosas una al plazo y dos al contenido hemos dicho que se ha dado el caso también que se tengan en cuenta las aportaciones de los colectivos sociales que hicieron sus

desarrollo reglamentario del derecho subjetivo a la vivienda y como decía

las políticas de alquiler público era un acuerdo del parlamento vasco

de eso con esa garantía que no se haga ni una sola vivienda para venta que se en serio la movilización de vivienda vacía que sea un eje prioritario que pongamos herramientas que pongamos también medidas fiscales estaremos atentos

lo podamos utilizar para hacer política para hacer política fiscal para movilizar la vivienda y para garantizar en definitiva un alquiler público un alquiler digno y un alquiler que se pueda

en estos momentos por tanto y acabo el acuerdo

de este parlamento vamos a estar encima tiene que tener reflejo

en la comparecencia va haber enmiendas destinadas a cada punto de esta resolución y espero que por lo menos esas puedan salir adelante eskerrik asko eskerrik asko

no abrir debates porque el acuerdo al que hemos llegado creo

y sobre todo será un buen acuerdo yo creo que además ha habido un intento por los grupos proponentes en este caso de intentar rebajar lo que en sus iniciativas originales ponía precisamente para facilitar este acuerdo cuando se aprobó la ley de vivienda bueno pues uno hubiese pensado por la trascendencia que algunos le dieron

y que se cerraba un debate con una ley de vivienda que había sido demandado durante mucho tiempo pero estamos un tiempo después de aprobada la ley de vivienda y seguimos debatiendo sobre la misma

de acuerdo con la señora otamendi que planteaba precisamente en una reconsideración

porque son dos cuestiones diferentes sobre las que pivota y además se ve en la propia enmienda a la que hemos llegado

están relacionadas con la vivienda las dos pero que son dos cuestiones diferentes la primera de ellas y sobre la que me voy a referir era sobre la política de alquiler de viviendas en alquiler y la política que al respecto debe desarrollar el gobierno vasco

en los últimos años hace diez años en el año dos mil ocho según datos del observatorio de vivienda solo un nueve coma ocho por ciento de los demandantes de primera vivienda se decantaban por el alquiler y casi

a cuarenta y cuatro años que demandaba una primera vivienda le interesaba en propiedad y hasta un treinta por ciento no se decantaba ni por uno ni otro sistema estos mismos datos en el año dos mil diecisiete eran

y solo una de cada tres personas de dieciocho a cuarenta y cuatro años que demandaba esa primera vivienda lo hacía en propiedad y

un treinta y seis por ciento perdón mientras que al restante veinte por ciento le era indistinto

con la demanda de la población vasca en general y de los inscritos

el porcentaje de solicitudes en alquiler alcanza el ochenta por ciento

vemos cómo el vuelco ha sido prácticamente total y por lo tanto pues desde las instituciones públicas debemos llevar a cabo medidas que impulsen el número de viviendas en alquiler no solamente porque es lo que demandan los ciudadanos vascos sino también porque la propia ley de vivienda

el gobierno vasco sea a través de una prestación económica dirigida al mismo fin por lo tanto tal y como

lo ha puesto de manifiesto también el propio ararteko y eso era lo que proponíamos nosotros también

nosotros poníamos más de dos años pues fueran destinadas a la ampliación del parque público

de un plazo en concreto porque hay que poner de manifiesto que el primero que tiene que hacer los deberes el primero en dar ejemplo debe ser el gobierno vasco existen en este momento viviendas en propiedad del gobierno vasco que están vacías

esto no casa mucho con la expresión de predicar con el ejemplo por ello solicitábamos y también está incluido

de vivienda y por lo menos el ochenta por ciento de los recursos presupuestarios deben ir

porcentaje que debe de ser ampliado en ejercicios sucesivos como es también necesario seguir potenciando programas como asap o como

hay que hacer notar que las previsiones no suelen cumplirse

como se pudo ver cuando se ofreció el balance del plan de vivienda

alcanzado los objetivos propuestos en dicho programa no sabemos

pues eran muy ambiciosos y se sabía casi desde el principio que no se iban a poder cumplir o por otras cuestiones en cualquier caso creemos que

adoptar las correcciones oportunas y dentro de esas

las fiscales que también aparecen en la iniciativa creemos conveniente o creíamos conveniente aunque no aparece tan especificado en la enmienda

con las diputaciones forales la aplicación de nuevas medidas fiscales que beneficiasen tanto a propietarios como inquilinos y que además además de poner

y luchar contra un posible fraude ocultación de rendimientos sacados del alquiler de viviendas y nos oponíamos

establecer un límite al alquiler establecer un precio marco o

van a poder limitar el precio del alquiler los socialistas esta cuestión no la veían clara hace unos meses claro que debía ser cuando sánchez era solo sánchez y no era presidente del gobierno y lo que antes no veía claro pues ahora que es presidente del gobierno lo debe de ver

en ese acuerdo poner límites a las rentas pero nosotros no estamos de acuerdo porque estas medias pueden logran el efecto contrario al deseado

al aumento también del tiempo que el contrato de alquiler tiene que durar como también está incluido en ese acuerdo en otros países europeos estas fórmulas se han aplicado y en esos países no han dado los resultados pretendidos así por ejemplo ciudades como paris o como berlín

conveniente pero en cambio establecer un límite obligatorio como digo creo que al final es verdad que la subida que

que se ha producido es cierto es así pero que es por la oferta y la demanda como he dicho en este momento los vascos y las vascas optan más por el alquiler que por la propiedad y por lo tanto

es establecer un índice obligatorio nos parece oportuno pero creemos que

que se desean con la fijación de ese importe obligatorio creemos además que

propositivas de medidas de fomento son la que darán lugar a la movilización de viviendas no ocupadas y a su puesta en el mercado y en este punto paso a hablar de otro del otro gran tema que es el de las mociones en la ley que es

necesario desde el principio porque muchos de los artículos de esa ley de vivienda dependían de su desarrollo reglamentario pero desde luego deviene absolutamente necesario después de la sentencia del tribunal constitucional de diecinueve de septiembre porque la ley establecía la posibilidad de actuar contra las viviendas que no cumplieran esa función social y poder actuar sobre esas viviendas que estuvieran desocupadas de forma continuada durante más de dos

en los términos previstos en la ley o en el desarrollo reglamentario de la misma en la ley preveía una serie de supuestos en el artículo cincuenta y seis

pero muchas de esas causas están sin definir y además pueden llevar a una gran casuística

pero qué causas especificas estamos hablando

qué es precio de mercado y por ejemplo si mi vivienda vale más pues porque yo la tengo

o porque la tengo en mejores condiciones que otras dentro de la misma zona

la desocupación establece que tiene que ser continuada ese continuada se puede interrumpir por ejemplo ocupándola veinte días esto también cómo se puede interrumpir esa desocupación también

como también se debe der resolver los términos de intervención

con relación al canon por ejemplo va a ser compatible con los recargos de ibi que se hace desde los ayuntamientos

que se puede aplicar en casos de acreditada demanda y necesidad de vivienda cómo se va

esa necesidad y esa demanda de vivienda hablábamos y habla en la iniciativa de los ayuntamientos es verdad nosotros cuando se debatía la ley de vivienda decíamos

sino que también las establecía a los ayuntamientos por lo tanto bueno pues los ayuntamientos tendrán que saber en qué van a estar implicados y cómo van a estar implicados

ya por último y acabo señora presidenta la verdad es que uno pudiera parecer que el mercado de viviendas vacías sobre el que poder actuar es amplísimo es infinito

uso de la vivienda en euskadi esta divide entre ocupadas de temporal o desocupadas dentro de estas últimas

dentro de las que no se incluyen las que estén en ruinas bien de estas últimas no están en disposición de serle aplicadas todas aquellas que no lleven desocupadas más de dos años

lo que supone un seis coma seis por ciento del parque total de viviendas las gestionables serian la mitad treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis es decir tres coma tres por ciento pero aplicando ese plazo más de dos años exigido por la ley serian veinte mil ochocientos cuarenta

y de estas las que están en condiciones de habitabilidad perfectas es decir las que pueden ser ocupadas ya sobre las que podría aplicar ya ese tipo de medidas

por ciento del parque de viviendas de eso es de lo que estamos hablando y por lo tanto yo creo que
eso también hay que ponerlo de manifiesto amaitu mesedez

que es necesario que se proceda por tanto en el menor tiempo posible al desarrollo reglamentario de esa ley tres barra dos mil quince que impulse el establecimiento desarrollo y ejecución de esa política de vivienda acorde

de manera que ese derecho subjetivo sea plenamente efectivo y no una simple manifestación de la ley eskerrik asko llanos andrea euskal sozialistak

una casualidad y que pone de manifiesto primero que existe una voluntad de acuerdo no solo por parte de los grupos que sustentan al gobierno sino también por los grupos de la oposición

estas iniciativas y que también la intención la voluntad del gobierno está en sintonía con todos los grupos parlamentarios representados en esta cámara

a mí me gustaría agradecer a todos los grupos que hemos participado en la elaboración de esta enmienda transaccional

que hemos aplicado porque yo creo que de alguna manera todos y cada uno de nosotros pudiéramos haber tirado hacia nuestro lado unos intentando apretar al gobierno en cuanto a los plazos

haciendo un ejercicio de irresponsabilidad de espejismo político y de vender falsas expectativas pero creo que ni a unos ni a otros

agradecer el esfuerzo que hemos realizado para llegar

creo que está muy ajustado a la realidad el acuerdo al que hemos llegado como bien han dicho los parlamentarios y parlamentarias que me han precedido esta enmienda transaccional está basada en dos bloques principalmente se ha querido priorizar todo lo relativo a las mociones que trataban sobre el desarrollo de la ley de vivienda y creo que se ha llegado a un acuerdo en tres puntos que yo considero que son fundamentales el primero

entendíamos que es imposible desarrollar el conjunto de decretos que conlleva esta

esta ley durante la presente legislatura pero creo que es muy importante que hayamos priorizado y que hayamos establecido

al desarrollo normativo de lo que viene a ser el cuerpo fundamental de la ley aquellas cuestiones

nucleares para que esta herramienta sea efectiva que siente los cimientos las bases para que esta ley pueda ponerse en marcha y pueda ser efectiva lo antes posible yo creo que es importante que se clarifique por una parte el nivel competencial las competencias que pueda tener los ayuntamientos clarificar cuál es el papel de cada uno de nosotros el señor martínez pedía liderazgo por parte del gobierno yo creo que ese liderazgo se está ejerciendo sobradamente y no solo

y ya se está llegando a acuerdos con muchos ayuntamientos en políticas concretas sobre todo en cuanto a vivienda vacía propiedad de esos ayuntamientos al hecho de poder empezar a promover ya políticas de alquiler interinstitucional está claro que no es todo lo que nosotros desearíamos pero creo que se está aprovechando bien el tiempo en tanto en cuanto todavía no tenemos un decreto que clarifique

en segundo lugar en cuanto al desarrollo normativo que afecta al derecho subjetivo de la vivienda creo que es un elemento fundamental y no menos complejo y creo que en este sentido el proceso participativo es muy enriquecedor no es menos cierto que también ha podido

ese proceso participativo en tanto en cuanto se realizan aportaciones que van a ser incorporadas a ese decreto también requiere no solo de un análisis sino también de informes preceptivos para poder incorporar con seguridad jurídica esos elementos a ese decreto y por tanto entendemos que esos nueve meses que

aprobarlo yo creo que es un tiempo entiendo que razonable para poderlo tener para poderlo analizar y para poder tener como decía un decreto con la suficiente garantía jurídica y el tercer punto todo lo referente al decreto normativo que va a establecer o que va a ir en torno a la clarificación

de lo que viene a ser la vivienda deshabitada yo creo que es un compromiso del gobierno importante que en nueve meses podamos tener un decreto de este tipo un decreto que va a regular un elemento fundamental de la ley

porque de por sí lo sea sino porque es un elemento que condiciona también a otros muchos elementos a otros decretos también de esta misma ley yo creo que

que estén recogidas en la ley que no tengan en el establecimiento de lo que es el concepto de vivienda vacía la implicación que puede tener eso en el resto de elementos en el resto de decretos por tanto entendemos que es una cuestión nuclear una cuestión muy importante que se debe de clarificar y que como decía

el cuerpo de la ley en sus características más importantes se podía haber corrido más como decía se podían haber achicado tiempos pero creo que esta ha sido

que ha tardado en tener un pronunciamiento por parte del tribunal constitucional y eso indudablemente ha retrasado y ha dificultado el desarrollo normativo de esta ley por tanto quizá lo más prudente no era correr lo más prudente era tomarse el tiempo suficiente para que todos los decretos normativos

o los recursos que se pudieran interponer no nos introdujeran en una dinámica de inseguridad jurídica que probablemente nos volvería

estos decretos para nada hubiera sido deseable para ningún grupo y sin duda alguna mucho menos para este gobierno y el segundo bloque fundamental

que hemos aprobado es el de las políticas de alquiler se ha priorizado en esta enmienda transaccional como decía toda la cuestión del desarrollo normativo pero creo que el acuerdo al que hoy hemos llegado los diferentes grupos parlamentarios aquí representados no es menos importante en lo referente a las políticas de alquiler porque yo creo que no es cuestión

hace mucho tiempo que está trabajando en aras a impulsar políticas de alquiler que sean innovadoras y sobre todo que respondan

el señor consejero nos expuso el día que hizo su explicación sobre los presupuestos de su departamento creo que hemos alcanzado

y creo que también hemos ratificado otro acuerdo que en su momento también ya lo adoptamos pero que creo que también era importante volverlo a poner hoy encima de la mesa como es la necesidad de continuar mejorando la integración operativa de las públicas en este caso de visesa y de alokabide creo que es importante que volvamos otra vez a traer el tema este creo que hoy no nos ha dado tiempo

sobre este asunto durante esta legislatura pero como decía fundamentalmente lo importante lo que hemos aprobado

a las políticas de alquiler el impulso políticas que de alguna manera nos garanticen que todo lo que el gobierno ya está trabajando sea efectivo primero teniendo una planificación que ya está recogida en el plan director de vivienda que eso va a requerir indudablemente de un respaldo presupuestario que esperemos que sea el suficiente para poder

a efectos y en este sentido apelo también al compromiso de los grupos parlamentarios de la oposición que a través de sus enmiendas no me cabe ninguna duda que van a barrer

en esta cuestión también en el establecimiento de medidas fiscales que entiendo que es muy importante y tenemos órganos que indudablemente tienen mucho que decir

arropar para poder impulsar esas políticas de alquiler como es también

de índices de referencia de precios del alquiler que sin duda aunque no sean de obligado cumplimiento creo que establecen unos baremos que también pueden redundar en beneficio de la consolidación de estas políticas por tanto creo que hoy hemos alcanzado un acuerdo que vuelve a apuntalar la política de vivienda de este gobierno

que durante la pasada legislatura se debatió y se aprobó en este mismo parlamento y en este sentido creo que es una buena noticia que una vez más todos los grupos parlamentarios

para colaborar con este gobierno en el impulso de esta ley de su desarrollo normativo y de las políticas que deben de acompañarlo eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

bien pues quiero darles dos alegrías una es que hay acuerdo pero bueno ya sabemos que eso no es suficiente

muy breve en primer lugar estamos hablando como ya lo hicimos en la interpelación hace un par de semanas la señora consejera la señora uriarte de la integración de la red pública

de enseñanza y después de esa interpelación

que tuvimos con la señora consejera decidimos presentar esta moción una moción que finalmente ha sido firmada a través de una enmienda de transacción y que

todos los grupos parlamentarios con este asunto hemos hablado en reiteradas ocasiones en el parlamento vasco han sido diferentes durante los últimos años las distintas iniciativas parlamentarias ha habido también reflejo en enmiendas presupuestarias

el mismo día también de la interpelación hubo un anuncio por parte del ayuntamiento de vitoria en relación con noticias en el sentido de la integración

interpelación que estábamos dispuestos a ayudar con una moción y este acuerdo parlamentario eso es ayudar al gobierno con una moción y qué dice esta moción en relación con ese proceso con esa definitiva

dentro de la red de enseñanza pública esta dice tres cosas tres cosas claras porque tres cosas donde se habla de plazos y en ese sentido

de la enmienda de transacción es que el parlamento vasco insta al departamento de educación del gobierno vasco a que formalice antes de finalizar el año dos mil dieciocho es decir

en pocas semanas el convenio sobre la integración del conservatorio municipal de danza josé uruñuela en la red pública de enseñanza

y la segunda es que el parlamento vasco también insta al departamento de educación del gobierno vasco a que el proceso de integración definitiva en la red de enseñanza

se produzca a la mayor brevedad posible dentro de dos mil diecinueve impulsando esa transición normalizada la estabilidad del centro algo que era lógico que era deseado y que todos veníamos exigiendo es decir en primer lugar el convenio en dos mil dieciocho en segundo lugar la integración en dos mil diecinueve

del gobierno vasco a llevar a cabo las actuaciones necesarias para habilitar la dotación presupuestaria necesaria requerida para la integración señora uriarte como usted ve le hemos ayudado

con nuestra moción y ahora con el acuerdo parlamentario por unanimidad así que tiene dos mil diecinueve
para hacer este mandato muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

arratsalde on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea todos los aquí presentes coincidiremos al menos a nivel teórico en el poder educativo de desarrollo humano y de valores que proporciona las enseñanzas artísticas

nos aportan numerosos beneficios tanto a nivel formativo como en el aprendizaje de otras áreas y a nivel de crecimiento personal y por ello es de suma importancia

disciplina que hoy abordamos se ofrecen infinidad de herramientas para desarrollar las capacidades socio afectivas que son

de las competencias básicas transversales además de beneficios físicos como psicológicos en esto todas estaremos de acuerdo sin embargo cuando hablamos de apostar hablamos también de apoyar de apoyar en no dejar morir los centros no ponerles barreras administrativas hablamos de apoyar el desarrollo y buena gestión

y sin trabas burocráticas todos los centros y todos sus niveles desde la formación elemental hasta niveles superiores y décimos esto porque a veces nos da la sensación de que este gobierno solo apoya las enseñanzas artísticas superiores

y de nada servirá apostar y apoyar musikene o dantzerti

se apuesta y se apoya también a los centros municipales donde se imparten niveles elementales de nada servirá apoyarlo

si no se apuesta y se apoya al conservatorio municipal

que es quien dota de alumnos y alumnas a dantzerti y es aquí donde centramos el debate de hoy en el conservatorio municipal de danza josé uruñuela de vitoria un conservatorio

ofreciendo a niños y niñas la posibilidad de obtener una formación profesional de calidad en estudios

un conservatorio municipal por el que desde este parlamento se llevan años peleando para su integración en la red pública vasca de enseñanza ya en la época del alcalde josé ángel cuerda se pedía la integración del conservatorio josé uruñuela pública escuchamos atentas el pasado pleno de control la lista de pasos que hay que seguir para que el conservatorio municipal pase a formar parte

y desde elkarrekin podemos nos hemos limitado a enmendar la moción que ha presentado el señor barrio desde la óptica de arrancar una fecha un compromiso firme por parte de este gobierno lo más importante creemos que está conseguido todas estamos de acuerdo

pase a formar parte de la red pública ahora bien urge que se aceleren los plazos

esta integración en los últimos meses y tras la jubilación de la directora

la escuela ha estado sometida a una incertidumbre nada deseable para un centro de prestigio como es el de josé uruñuela

que garantizase una buena gestión del centro para que continúe siendo un centro de referencia en las enseñanzas profesionales ante la situación actual y hasta la integración de la misma en la red ha sido como bien ha explicado el señor barrio posible el acuerdo porque todos los grupos como no podía ser de otra forma estamos de acuerdo con una reivindicación histórica del conservatorio josé uruñuela y ahora

que ahora sí el departamento pueda cumplir con los plazos a los que se le insta y que se haga realidad para nosotras hubiera sido importante que dicha integración se materializase al inicio de este curso hubiese supuesto una mejora en las tasas a las que las familias

no obstante estamos contentas con el acuerdo alcanzado y solo esperamos el cumplimiento del gobierno besterik ez

espero que esto no sea una excepción que haya que poner en un marco sino que se pueda convertir en regla bueno vamos a ello el conservatorio de danza josé uruñuela es conocido y reconocido por sí mismo por su trayectoria y por su educación

funcionando ofreciendo la posibilidad de obtener una formación profesional y de calidad

y secundaria obligatoria es un referente tanto en euskadi como fuera de euskadi además de hacer de vitoria una ciudad de interés turístico para el resto de ciudades europeas

en sus dos niveles el elemental con cuatro cursos y el profesional con seis cursos

de bildu y se aprobó una enmienda transaccional suscrita por los proponentes de la proposición por el grupo nacionalista y por el grupo socialista que constaba de dos puntos en el primero se instaba a reconocer el patrimonio y la trayectoria

y en el segundo se instaba al departamento de educación política lingüística y cultura que se acordase con el ayuntamiento de vitoria en el plazo de un año un itinerario que condujese a la integración del conservatorio en la red pública dependiente del departamento evidentemente esto no ha sido así hasta la fecha

a pesar de que se hayan dado pasos para avanzar en esa integración lo cierto es que hasta hoy no había llegado a culminarse entendemos que las negociaciones no son fáciles entendemos que todo conlleva un tiempo que han de concretarse muchas cuestiones adaptando las medidas necesarias

fuerzas políticas en este caso todas ellas las del parlamento estamos de acuerdo en cómo ha de materializarse el tema y es que el departamento de educación asuma la titularidad y el conservatorio se integre al referido a la red pública de enseñanza y no hacemos con esto más que reconocer

que el gobierno integre este conservatorio en su red pública es una garantía para el conservatorio y además nos consta que es bien recibida por los grupos municipales del ayuntamiento de vitoria que también está de acuerdo con la integración en la red pública de enseñanza y queremos ver por fin materializada esta voluntad del gobierno

para que sea real que es lo que todos deseamos nos alegramos de que el trabajo de estos años entre ambas instituciones dé sus frutos y que por fin este convenio de integración

la transacción alcanzada y que el proceso de integración definitiva se dé a la mayor brevedad posible yo con esto termino ya de paso les anuncio que no tengo intención de intervenir en el segundo turno

epaiketa justurik eta defentsarako gaitasunik gabe recientemente activistas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres en el salvador

mujer salvadoreña encarcelada en el centro penal de san miguel acusada de homicidio agravado en grado de tentativa por el hecho de haber tenido un parto extra hospitalario cuyo procedimiento judicial estaba previsto celebrar

aplazado por falta de asistencia de la fiscalía mientras imelda isabel cortez palacios sigue en prisión injustamente horregatik guztiagatik